creo que cada grupo ha podido exponer sus opiniones y sus posiciones al respecto

al gobierno y mostrar su confianza en el señor darpón cosa que

en todo caso es evidente que si la forma de actuar de este gobierno hubiera sido la forma de actuar de otro gobierno que no estuviera apoyado por el grupo nacionalistas vascos señor orbegozo usted no hubiera hecho tanto la rosca como ha hecho escasos minutos y hubiera reconocido y hubiera llamado la atención al gobierno en relación

y al gobierno que ha incumplido plazos y le hubiera recordado que este instituto a día de hoy no ha logrado la acreditación todo esto es lo que usted le hubiera dicho al gobierno

al gobierno mostrar su confianza en el consejero y hablar

del edificio pero más allá de este tipo de discursos sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora lo sabemos todos los grupos el gobierno ha incumplido

lo que prometió el gobierno vasco ha incumplido un mandato parlamentario se está produciendo un retraso en la acreditación en relación a lo que se prometió

indispensable para alcanzar el objetivo que todos compartimos habla de incumplimientos y realiza recomendaciones a pesar de que el portavoz

que realiza recomendaciones pero es que realiza recomendaciones y recuerda una serie de incumplimientos muchos incumplimientos decenas de incumplimientos por supuesto subsanables pero incumplimientos

es que tome las medidas necesarias para corregir esos incumplimientos y esas deficiencias

el objetivo por lo tanto este informe no habla solo de recomendaciones que también y son muy importantes evidentemente habla de incumplimientos y de deficiencias que deben ser corregidas en resumen termina este informe existen limitaciones a nivel documental

por cierto qué avances se han producido desde la visita qué correcciones se han impulsado durante el último mes y medio

si no lo puede explicar a día de hoy evidentemente pediremos al consejero que en la comparecencia que se pueda producir cuanto antes explique

y qué es lo que va a hacer para lograr la acreditación cuanto antes lo cierto es que el gobierno vasco ha estado paralizado en este asunto

y se trata de despertar hay que despertar entre todos tenemos que conseguir despertar a este consejero y a este gobierno y obligarle a actuar con

no se trata ya de prometer que se actuará con responsabilidad ni de renovar compromisos etéreos o evanescentes no se trata de

se han producido ya incumplimientos y retrasos y por lo tanto esta moción es para poner las pilas al señor consejero para que no nos regañe tanto

en relación a este asunto yo creo que el señor consejero con la ayuda de todos nosotros puede lograrlo parece en fin finalmente que el gobierno vasco

y rechazará esta iniciativa bueno el resto de grupos que hacemos oposición creo que tenemos las ideas muy claras creo que esta moción recoge lo fundamental

en su enmienda y salga o no aprobada nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo para que el consejero

sus compromisos ya digo que de eso se trata no creo que tampoco se trate de ver qué es lo que hizo el gobierno anterior al menos no es lo principal

mirar hacia delante corregir cuanto antes las deficiencias y que podamos lograr la acreditación que creo que es el objetivo de todos nosotros como decía

para obtener financiación y poder desarrollar proyectos de investigación que situarían a nuestra comunidad autónoma a la vanguardia de la investigación biosanitaria este es por lo tanto

los tres grupos yo agradezco al grupo popular y al grupo socialista la firma de esta transaccional nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

casi todos los grupos han mencionado su preocupación por este retraso

el único grupo que la ha incorporado es eh bildu que dice el parlamento ante el retraso de la acreditación y en definitiva puesta en marcha del instituto de investigación biocruces

a la dirección de investigación e innovación sanitaria y a la dirección de biocruces dos el parlamento solicita la comparecencia en el plazo de un mes del consejero de salud de la directora de investigación e innovación sanitaria y del director de biocruces somos los únicos que lo incorporamos en nuestra enmienda ahora aparece la enmienda de transacción

a fin de que expliquen las razones del mencionado retraso que ustedes no lo dicen y nosotras sí

con todas las garantías la acreditación ante el instituto carlos tercero y además deberán explicar

a cabo usted no sabe señor maneiro qué es lo que opinamos sobre la enmienda transaccional ha hablado usted con nosotros no verdad entonces

esta transaccional decae es única y exclusivamente por su culpa el culpable es el proponente de la moción

es usted el único culpable entonces da la impresión de que poco le importa el recorrido de sus propuestas el recorrido de su moción cuando no quiere negociar y le importa bastante poco que salga adelante o no salga eso es así y lo demuestra usted todas las semanas si quiere luego lo hablamos tomando un café esto lo hace usted todas las semanas lo único que pretende es sacarse una foto aquí no firmando con nosotros para marcar no sé qué posiciones en madrid los problemas de los ciudadanos y ciudadanas vascas le importan muy poco

hubiera seguido con su moción con la negociación intentando que esta transaccional saliese adelante

en contra de esta enmienda transaccional no sé qué argumentos tendrán ustedes para votar si se llega a votar la nuestra para votar en contra de la nuestra

compromiso decidido con este proyecto con su acreditación pues no le están saliendo las cosas muy bien a este

por una parte no se están cumpliendo las previsiones que ustedes mismos nos plantearon y nos explicaron en esta comisión y los pasos que se tenían que ir dando y que tenían que ir saliendo bien para conseguir esa acreditación y tampoco se cumplen los

y además acuerdos suscritos en este caso un acuerdo en concreto en el que se nos decía que la acreditación estaría y se instaba al departamento para que así fuera

el año dos mil trece no ha sido así y eso digo que el acuerdo fue suscrito

y el grupo eaj pnv que apoya al gobierno por lo tanto quiero decir que mal les están saliendo las cosas o falta de previsión

pero desde luego las cosas no les están saliendo ni bien ni como ustedes tenían

en firmar esta enmienda de transacción creo que hemos hecho un esfuerzo todos

original precisamente para que el grupo que apoya al gobierno pudiera apoyar este texto no veo cuáles son los inconvenientes de que el partido nacionalista vasco

que dice lo siguiente en el primer punto habla de que se subsanen a la mayor brevedad los incumplimientos y aplicar las recomendaciones recogidas en el informe de la visita

y la necesidad de subsanar esos incumplimientos en aras a cumplir el real decreto sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria y poder solicitar la acreditación por lo tanto no veo la verdad me preocupa la posición del partido nacionalista vasco porque al no suscribir este primer párrafo bueno y ya el segundo quiero decir que me preocupa porque entonces ustedes qué le están haciendo

nos gustaría saber qué pasos se están haciendo y en ese sentido ya hemos anunciado que vamos a pedir la comparecencia nuevamente del señor consejero de la directora de innovación e investigación y del director

es que llevamos un año prácticamente perdido con este asunto nos preocupan mucho los hechos y los acontecimientos relacionadas con biocruces la dimisión de la dirección científica nos preocupa que ustedes

pasos que se iban a seguir y no se están cumpliendo nos preocupan que ustedes

y no sea así por lo tanto yo le diría señor consejero que menos autocomplacencia es un consejo si me lo permite menos estar a la defensiva porque me da la sensación y releyendo ya las intervenciones no oyéndole ya

tanto en comisión como en pleno está usted a la defensiva pero si todos estamos interesados en que este proyecto siga adelante todos estamos interesados por lo tanto

hoy aquí del grupo nacionalista vasco no sé si de motu propio o también marcada

esta enmienda de transacción yo les diría que se pongan manos a la obra y que desde luego subsanen esos incumplimientos de lo que nos darán cuenta en la comisión que se sustanciará esperemos que pronto

podamos avanzar pero es que no sé si ustedes están poniendo toda la carne en el asador para avanzar y lo cual desde luego para el grupo popular

muy brevemente para señalar que desde luego en este momento no hay mimbres para el optimismo hay un montón de incumplimientos

a la mayor brevedad pero también queremos información acerca de esas deficiencias cómo se está trabajando y cómo se está avanzando también nos preocupa

clara la acreditación de nuestro instituto realmente tampoco va a acordar que los fondos que ya adelantó permanezcan en euskadi

aunque aquí se minimiza acerca de la necesidad de un nuevo centro no hablamos de tamaño de centro ni si tiene que ser un corte inglés o un subterráneo lo que sí en la misma comparecencia del treinta de septiembre el señor consejero

a pesar de la reutilización de todos los espacios disponibles de los que dispusiera cruces en ese momento a pesar de todo

por tanto no sé a qué viene decir que ya se cumple con el edificio

entre ellas como usted sabe bien la dotación de un espacio para la construcción

por ejemplo y seguro que tiene otras necesidades de expansión el propio hospital de cruces y que no puede dotar todos sus espacios disponibles para la construcción o para la cesión al instituto de biocruces

en la propia comparecencia de septiembre era necesario un nuevo edificio usted decía que más pequeño que el que estaba diseñado originalmente pero hacía falta un nuevo edificio

porque hay voluntad de construcción pero además hace falta resolver otra serie de deficiencias

de investigación que esté dentro de los criterios de excelencia que no décimos que no se esté investigando en cruces y que determinadas investigaciones sean estupendas

lo que creemos es que la mejor manera de facilitar la investigación y la consecución de patentes es decir de aplicación de las investigaciones

es la adquisición de un instituto de investigación por lo tanto

la consecución y la resolución de las deficiencias que haya para conseguir

por tanto señor consejero tome nota de las cosas que hoy se han dicho aquí porque yo resumiría en preocupación por los grupos pero también apoyo para que usted trabaje en la adquisición la consecución de los objetivos supere todas las barreras y deficiencias que se hayan

como digo para conseguir la acreditación si usted tiene necesidades de modificación de presupuestos

situación que la acreditación del instituto biocruces exija tráiganoslo que contará con nuestro apoyo nada más y muchas gracias eskerrik asko

con que upyd encima o el señor maneiro nos reprocha que

que hemos hecho ha sido a parte de hacer la pelota hemos sacado una y otra vez el tema del edificio pero si su discurso ha pivotado

sin edificio no hay acreditación ha sido recurrente ese argumento o sea se han basado en eso hasta ahora ahora

leen aquí lo interpretan como ustedes les da la gana y sin embargo no mencionan

con los recursos y espacios físicos necesarios para la acreditación entonces es anteriormente si ya sabíamos que se contaba con los recursos por qué no se inició el procedimiento

lo que no entendemos y lo que los tres grupos han estado planteando reiteradamente en esta cámara

que se aniquilaba la investigación sanitaria en euskadi si no se acometía o si no se construía un nuevo edificio

no ser cierto tal y como lo recoge el propio informe informe que vuelvo a decirlo no hubo oportunidad para detectar esas deficiencias a las que se ha aludido aquí porque no se hizo nada porque

firmaron un acuerdo de legislatura y en tres años y medio no se ha conseguido o no se ha avanzado nada en el procedimiento de acreditación y ahora es cuando le entran las prisas

por lo tanto aquí la pregunta es esta si estaba todo hecho

cómo no se hizo ni siquiera la visita previa es algo que no cuadra

cómo lo sabían si eso lo dice el informe que no era necesario

por qué se ha firmado el convenio con la universidad del país vasco ahora por qué es ahora cuando está la universidad del país vasco representada en los órganos de gobierno y no antes

para la acreditación beraz bukatzeko

gracias señora presidenta debatimos hoy esta moción que es consecuencia de la interpelación sustanciada en diciembre del pasado ejercicio

en un contexto político muy concreto y determinado contexto en el que lamentablemente asistimos a un goteo incesante de excarcelaciones de miembros de eta

asimismo se produjo un rebrote muy notable de los actos de kale borroka como forma de protesta al más puro estilo abertzale

fueron días dolorosos y de pesar a los que a las imágenes por las excarcelaciones de presos de eta

o como simples actos de recibimiento y en coherencia con esta filosofía con un claro sesgo político tuvimos que asistir a la inacción por parte de la policía autónoma a todas luces

a nuestro entender su inacción fue premeditada e intencionada respondiendo a las directrices políticas emanadas desde el gobierno vasco nuestra crítica lo quiero dejar bien claro desde el principio no va en ningún caso dirigido a los profesionales

a los que sin duda queremos y debemos poner en valor sino hacia los directores espirituales que toman esas decisiones queremos que quede claro desde aquí que la ertzaintza es una policía absolutamente profesional con capacidad

de prevención y de persecución del delito los que no sé si tienen esa intención son otros no sé si fueron actos en los que se incurrieron en algún tipo penal

cuestión como dije entonces que deben dilucidar los tribunales de justicia pero lo que no nos cabe ninguna duda es que fueron actos de humillación y de descrédito para las víctimas

para intuir que este tipo de actos teniendo en cuenta los antecedentes y sus protagonistas

por tanto señorías hubiera sido muy sencillo si hubiera existido un mínimo de voluntad política que no existió haber adoptado las medidas preventivas necesarias

la imagen ética de euskadi y que hieren emocionalmente a las víctimas del terrorismo

democrática nos parece inaceptable y que se califique como acogimiento caluroso de la imagen de euskadi

por el asesinado de un niño de dos años fabio moreno que fue recibido pasillos de honor con antorchas y acompañados con fuegos de pirotecnia en un acto que duró más de tres horas no podemos permitirnos el lujo de consentir y ofrecer una imagen de normalidad frente a las muestras de júbilo con las que han sido recibidas personas condenadas por la comisión de delitos de gran gravedad nos empobrece y minimiza nuestro bagaje ético y nos deshumaniza como sociedad

la devalúa como garante de los principios y valores democráticos la ertzaintza debe estar al servicio de la democracia y de los demócratas

a estrategia y cálculos políticos del gobierno de turno no puede ser una policía de vitrina que asista impávida a estos actos de recibimiento

que responda a una filosofía política que como he dicho considera estos actos de humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo como actos de calurosa acogida

de un miembro de eta es planificada de forma pormenorizada por parte de la propia organización conscientes de que los presos son un elemento fundamental en su estrategia los conocidos como ongi etorri son actos de pura propaganda que pretenden convertir en héroe a quién no es más que un simple villano podemos admitir que se nos presente como mártires del pueblo vasco a quienes han convertido durante décadas la vida del conjunto de los vascos y de los españoles en un martirio colectivo

tiene que evitar esto por eso lo proponemos en nuestra moción

en nuestro país durante el pasado ejercicio y que sobre todo tuvieron un claro repunte

la señora consejera durante la interpelación expresó que durante el ejercicio dos mil trece se habían producido doscientos seis actos de violencia callejera y que catorce

a la hora de calificar si un acto de violencia callejera está o no relacionado con la kale borroka

como actos de kale borroka trece durante el año dos mil trece

los actos de sabotaje a nuestras sedes de barakaldo amurrio getxo o san sebastían que no figuren los ataques al ayuntamiento

batzoki de barakaldo o la quema de mobiliario urbano y de contenedores que se produjo durante aquellas fechas

quizás para algunos este tipo de actos vandálicos no se encuentran vinculados a la kale borroka

a esta dirección que a cualquier otra nos da la sensación de que algunos están más preocupados

tratando de ofrecer de esta manera una imagen de absoluta normalidad más preocupados por esto que por prevenir y perseguir este tipo de actos y no somos expertos policiales para establecer o imputar determinadas autorías

han sido los autores materiales intelectuales de estos actos de violencia callejera y nos llama poderosamente la atención que precisamente ahora

sin ligación política alguna que eligen como forma de diversión para los sabados por la noche

cuando este tipo de prácticas ha estado monopolizado durante décadas por los acólitos de eta

entre nuestros jóvenes sin adscripción política una nueva forma de diversión nocturna que está basada en los sabotajes

callejeras quieren que aceptemos parece ser que una buena parte de la juventud vasca ha importado y ha asumido como propio ese modelo festivo nocturna que hasta ahora pertenecía

de acuerdo a sus intereses y administrando perfectamente los tiempos es más que evidente que en función de la presión que quiera ejercer sobre el gobierno y sobre la propia sociedad

conveniencia y eso lo tenemos que tener muy presente y eso lo tenemos que evitar y si queremos realmente

lo que no se puede es utilizar el maquillaje y la cosmética porque estos se van a acabar derritiendo

en este asunto como en tantos otros los poderes públicos no podemos hacernos trampas en el solitario y la única

la prevención la persecución en definitiva la lucha policial

porque sé que me van a hacer trampas como intentó hacérmelas la consejera quiero volver a poner en valor

o poner en solfa la labor de los profesionales policiales en absoluto todo lo contrario pero es evidente que nuestra policía en ocasiones

marcados por el gobierno vasco imágenes como las difundidas

desde luego no contribuyen en nada a ofrecer una imagen de imparcialidad política que a nuestro juicio debe primar entre los responsables de la labora de nuestra policía es evidente que estamos en un nuevo tiempo

pero como también he expresado en muchas ocasiones no estamos en el tiempo es evidente que tenemos que plantearnos el futuro desde luego pero ello no puede suponer olvidarse del pasado y es evidente que las instituciones tenemos que prevenir perseguir y combatir los últimos coletazos del terrorismo se niegan a eliminar el estado de derecho no puede bajar la guardia no puede relajarse y no puede tolerar ni el más mínimo residuo de intolerancia eta ha sido derrotada claro que ha sido derrotado pero su derrota no ha sido fruto de su conversión ética

a la convicción y al empuje de nuestro estado de derecho su derrota debe ser completa y para ello desde los poderes públicos no podemos ofrecer muestras de flaqueza en este

por ello también en nuestra enmienda de transacción

eso que se persiga la kale borroka hasta ahora hemos ganado en todas las metas volantes a eta nos queda únicamente cruzar la meta definitiva para ganar la última etapa la clasificación general

pero para ello necesitamos el compromiso de todas las instituciones y de todos los demócratas

no podemos aplicar criterios de comprensión identitaria ni parámetros de flexibilidad política ni instrumentos de tolerancia ideológica que con eta se ha mostrado

presidenta evidentemente estábamos de acuerdo con la moción planteada por el grupo popular es una cuestión al fin y al cabo de decencia democrática es una cuestión de defender las libertades públicas es una cuestión de defender la ideológica de cada uno de los ciudadanos vascos es una cuestión de defender

parlamento se comporte de una forma decente y diga no a la kale borroka y condene la kale borroka y diga no a los actos de enaltecimiento a presos de eta excarcelados y condene tales actos de enaltecimiento

un parlamento que quiera ser llamado decente sin embargo parece que en los últimos tiempos y siempre que hay una mayoría nacionalista y especialmente en los últimos tiempos ya digo parece que es imposible que este parlamento condene a eta condene los actos de kale borroka y exija a la consejera al departamento y al propio gobierno vasco que impida que se pueda realizar ningún tipo de homenaje o enaltecimiento a presos excarcelados o a la propia trayectoria de la banda terrorista hay una mayoría nacionalista por lo tanto que impide que se produzca esta

que va a ser de nuevo la realidad del día de hoy por lo tanto absolutamente de acuerdo con la moción planteada a la que nosotros hemos querido incluir

contundente de los actos de violencia callejera registrados en los últimos tiempos en varias localidades de euskadi por ser un ataque

ideológica y ciudadana enmienda de adición que ha sido incorporada a esta enmienda de transacción que se someterá a votación de nuevo vista

de otros grupos y en concreto la enmienda del grupo nacionalistas vascos de nuevo el partido nacionalista vasco en coherencia con su trayectoria histórica

y en este caso trasladar estos asuntos al cuarto oscuro de la ponencia

que no tiene otros objetivos que hablar

hablar de los presos de eta hablar se flexibiliza la política penitenciaria o hablar de cómo se acortan los plazos para que los presos de eta salgan antes a la calle esto es lo que básicamente propone y quiere que se haga en esa ponencia

la defienden nosotros no vamos a estar en ese cuarto oscuro que representa

no vamos a estar y creo que además nuestra posición coherente durante todo este tiempo durante todos estos meses ha condicionado claramente al partido popular y al partido socialista de euskadi creo que la posición coherente de upyd de no querer estar en esa ponencia ha hecho también que el partido popular se replantee estar y al propio partido

sonría saben que es así saben que es así ponencia no sirve para derrotar a eta una derrota por cierto que todavía no se ha producido señora llanos la derrota

sigue pendiente qué es lo que hay que conseguir qué es lo que hay que hacer para lograr ese objetivo cumplir y hacer cumplir la ley aplicar

defender la democracia defender las instituciones democráticas contar y recordar los hechos ocurridos detener a los delincuentes

hacer justicia esto es lo que debe hacerse para derrotar a la banda terrorista y a sus amigos políticos y esto hay que exigirle al gobierno vasco y al gobierno de españa la pregunta es de nuevo este parlamento no va a condenar los ataques de kale borroka

a la sociedad de nuevo una mayoría nacionalista parece que va a impedir una declaración contundente de condena de la kale borroka y de defensa

de nuevo una mayoría nacionalista va a impedir que podamos pedir al gobierno vasco que se impidan actos de enaltecimiento del terrorismo no es en absoluto un tema menor el partido nacionalista vasco quiere quitarle importancia a un asunto

sabemos lo que eta y su mundo han provocado en euskadi sabemos el daño inmenso que han provocado más de ochocientos asesinados

miles de extorsionados miles de personas expulsadas del lugar donde vivían un cálculo por lo tanto humano incalculable toneladas de odio contra la sociedad democrática familias rotas y además de eso un coste económico y material que algún día calcularse el coste económico provocado por eta los empresarios que decidieron marcharse los puestos de trabajo destruidos

el talento que ha emigrado durante largas décadas como consecuencia de las actuaciones de eta y de sus cachorros cuando actuaban y actúan en actos

que ha generado la pregunta es por lo tanto cuánto nos ha robado eta y sus amigos a la sociedad vasca el desarrollo económico que ha impedido el bienestar que ha lastrado por lo tanto

evidentemente estamos hablando de vidas de familias rotas de dramas personales y familiares y ya digo un coste económico

no a todo esto tantas veces como cualquiera de los grupos nos lo proponga en este caso ha sido el grupo popular tenemos que decir que no a todo esto tenemos que condenar todo esto no podemos mantenernos impasibles como el partido nacionalista vasco o el gobierno vasco

y su profesionalidad de la que nadie duda y otra cosa es la dirección política y el discurso en este caso que no es lo suficientemente contundente ni mucho menos del vasco no podemos mantenernos impasibles se necesita una posición activa no podemos rebajar nuestras exigencias democráticas efectivamente se trata de prevenir combatir y perseguir a los delincuentes

evidentemente pero también de esto debe hablarse siempre que cualquier grupo lo proponga porque es un tema importante quizás no hacen falta discursos muy extensos ciertamente al fin y al cabo está todo dicho en relación a esta cuestión este mismo asunto fue debatido hace

en bastantes ocasiones aunque todavía no hemos conseguido esa condena unánime de este parlamento a eta y a todo lo que representa por lo tanto se trata y nosotros nos negamos a claudicar en ese empeño se trata de condenar estos actos

y al gobierno vasco y al partido nacionalista vasco que los impida se trata de impedir actos de enaltecimiento y se trata de mostrar nuestra cercanía a las víctimas del terrorismo tantas veces como sea necesario en fin no podemos estar

positiboa eman nahi diogu por lo tanto no vamos a entrar en ninguna provocación en ningún intento de sobreactuación ya lo dijimos no vamos

denominado como actos de exaltación del terrorismo incluso cuando la propia audiencia nacional ha venido a desmentir acusaciones que se han realizado en esta cámara pactando por parte del partido popular como por parte de upyd no vamos a asistir

a partir de ahora ni el partido nacionalista vasco tampoco impávido ante ninguna acción violenta

por lo tanto no vamos a entrar en esa provocación desde luego defiendo absolutamente la voluntad política la dirección no espiritual la dirección política del gobierno vasco sobre la ertzaintza en la lucha contra eta y contra la kale borroka y contra la violencia contra todo tipo de violencia

no creo que tenga que dedicar tiempo a desmentir lo que son exageraciones sobre actuaciones yo podría entrar por ese camino señora llanos y podría dedicarle a usted parecidas descalificaciones

la hemeroteca reunir las descalificaciones que recientemente han hecho muchas asociaciones de víctimas muchos medios de comunicación

de este país a su partido político y al gobierno del estado en el mismo sentido podrían servir las críticas que usted ha realizado al partido nacionalista vasco se las han aplicado a ustedes

las asociaciones de víctimas y no voy a entrar por ese camino porque no es ese el planteamiento que defendemos por lo tanto solo le digo que cuando se cree y se alimenta un monstruo acaba volviéndose contra él y usted lo sabe bien

el parlamento vasco ya condenó a eta lo ha hecho en multitud de ocasiones

y en esta legislatura también el veinte de marzo en pleno monográfico lo hizo y por lo tanto eso es lo que compromete a este parlamento y a este grupo parlamentario por lo tanto al señor maneiro que además no está

el cúmulo de descalificaciones de insultos de porquería de difamaciones que ha pretendido dedicar el partido nacionalista vasco porque se caen por su propio peso

en el país vasco en el nuevo tiempo que se respira sin la violencia activa de eta hay personas que no quieren evolucionar nuestra obligación es evolucionar pues

considere que para nosotros es un tema menor este en cualquier caso

para repetir cosas que se han dicho muchas veces en esta cámara que nosotros los socialistas hemos dicho en numerosas ocasiones nuestro grupo nos vamos a circunscribir al epígrafe y al texto resolutivo de la moción que nos ha presentado el pp y al texto de la enmienda

upyd sobre esos textos nosotros no tenemos anda que objetar

se han aprobado en esta cámara y por lo tanto nuestro grupo también en esta ocasión vamos a votar afirmativamente a esos textos que en repetidas ocasiones nos hemos manifestado

sinceramente vienen a ser como un recopilatorio

a mí me gustaría decir cuatro cosas con respecto a la kale borroka primero

hizo que desaparecieran los espacios de impunidad en los que se desenvolvía la kale borroka como segundo que producto de esas acciones y otras que se han seguido desarrollando hoy podemos decir

gracias en nuestro país tercero que quienes en otro tiempo alentaron esa actividad delictiva hoy al menos en declaraciones públicas no lo asumen y cuarto que alimentada la bestia cuesta mucho reducirla y hacerla desaparecer esa es una de las cuestiones entre otras que tiene pendientes la izquierda abertzale para contribuir a la democratización

kale borroka violencia callejera acciones de sabotaje a sedes quema de mobiliario

la razón los métodos de la kale borroka toman las calles de burgos

la kale borroka escuela de radicales del barrio de gamonal a alcorcón

la violencia de la izquierda obliga a cargar a la policía en alcorcón en una batalla campal posteriormente habla de la kale borroka el país

aguirre compara los scraches con el matonismo de los seguidores de eta cifuentes vincula la plataforma contra los desahucios con grupos filoterroristas

o da imágenes de la kale borroka en la complutense

libertad digital hace un artículo kale borroka a la catalana

estatua sutan dago hay un concepto en derecho penal al estimar la autoría

a quién beneficia yo creo que hoy está claro cuál es el grupo que ha querido hoy recurrir a unos insignificantes residuales de autoría no reconocida para intentar sacar algo de rendimiento político unos datos

en la memoria del dos mil siete en ese epígrafe aparecen doscientos cuarenta y tres denuncias

la memoria del dos mil doce desaparece el epígrafe si bien se mencionan veintidós casos

en el dos mil trece han sido aún menos según algunos datos que aporta la consejería de seguridad diciendo que son en torno a los trece casos se puede hablar de repunte se puede hablar de un rebrote al estilo abertzale señora llanos no sé qué criterios policiales empleará para

o si por el contrario corresponden a nuevos grupos antisistema también un término empleado por la propia consejera delimitando una especie de kale borroka de nuevo cuño

a miles de jóvenes vascos bajo el concepto bajo la bandera de conveniencia de la kale borroka en la figura de arkaitz

por hechos absolutamente intrascendentes una vida truncada un desenlace irreparable frente a hechos irrelevantes contra mobiliario público en unos

ocurridos hace muchos años en otro contexto en otras circunstancias una insustituible vida humana mientras el bien jurídico protegido por un derecho penal excepcionalizado exacerbado y alocado para este derecho penal bienes materiales de escaso valor la represión a ese fenómeno denominado kale borroka tiene su consecuencia última en de arkaitz bellón una víctima mortal de una política punitiva que ha incluido la tortura en el momento de la detención la imposición de desproporcionadas penas

el encarcelamiento a cientos de kilómetros de su lugar de origen repetidas palizas y ataques violentos por parte de funcionarios en algeciras en dos mil ocho

el año dos mil doce un grave accidente de sus familiares

por último la muerte por causas que todavía no han sido

causas en cualquier caso imputables a la administración a la institución de la cual dependía y la cual debía de velar por su integridad física todos los ingredientes para un escándalo una radiografía de una política punitiva

que solo se puede calificar de criminal a esto conducen sus recetas a esto conduce su intransigencia a esto conduce

gracias de nuevo señora presidenta gracias al partido socialista por su apoyo y upyd por la firma de la enmienda de transacción

no voy a perder mucho el tiempo porque una vez más ha hecho en esta tribuna un ejercicio de cinismo al que bueno una ya está acostumbrada pero que cuesta

a pesar de la costumbre usted habla

utilización de una serie de medios contrarios a respetar los derechos y libertades de los demás pero qué es la kale borroka lo sabemos todos en este país lo sabemos todos ahora eso sí usted parece que ahora es un rebrote

usted dice que no hay tal rebrote pero por supuesto ha vuelto a decir que en un momento determinado y en un contexto determinado

porque lo ha dicho aquí ese es su mirar hacía delante reivindicar continuamente el pasado y decir que estaba justificada esa violencia callejera y por supuesto presentar

el depósito de armas las coacciones los daños y el incendio de autobuses poniendo en riesgo la vida de los demás

por el contexto en el que estábamos presentar como héroe y culpar al gobierno

de lenguaje absolutamente manipulado y que nada tiene que ver con el que hablamos los demócratas con el que hablamos los demás que no voy a perder más el tiempo con usted señor iturrate es que de verdad y sin ánimo de que me acuse de teatralizar porque cada vez que nosotros aquí le exponemos determinadas posiciones

ya están ustedes utilizando cada vez más ya es un recurso la ponencia como una excusa

como un parapeto para evitar decir aquí

nunca debió existir que no se pueden utilizar medios violentos por qué hay que decir eso ahora en la ponencia por qué no se puede decir aquí esta es la máxima representación de los ciudadanos vascos

en la ponencia por qué porque quieren ustedes mantener esa ambigüedad esa equidistancia calculada entre

lo que siempre han condenado pero sin producir demasiado descontento a los señores de bildu por esa equidistancia es por lo que hay que llevar todo a la ponencia porque yo ya le digo

no entiendo de nuestra moción qué parte el partido nacionalista vasco no

parte que se pongan todos los medios humanos y materiales para prevenir los actos de kale borroka así como los actos de homenaje

no se pudieron impedir porque no estaban avisados o no se impidieron porque se consideraba que no se tenían que impedir por qué no pueden estar

y lo tienen que votar en la ponencia por qué no pueden votar aquí la última parte

registrados en varias localidades de la comunidad autonoma del país vasco por ser un ataque inaceptable a los más básicos principios democráticos

y ciudadana por qué por qué eso hay que hacerlo en la ponencia

por qué no se puede hacer aquí ya digo con luz y taquígrafos a la luz de todos qué problema

de verdad produce auténtica pena ver este retroceso y yo le digo mire usted ha dicho que a nosotros nos critican nosotros asumimos las críticas y las respetamos

tranquilos porque nosotros seguimos llamando a la kale borroka kale borroka al enaltecimiento del terrorismo enaltecimiento del terrorismo a la humillación de las víctimas humillación de las víctimas

ahora igual que antes ahora igual que antes

esta situación evidentemente es mejor que la que hemos vivido otros años pero por qué señor iturrate por qué y gracias a quien no gracias a estos señores ni gracias a eta no

gracias a perseguir todos esos actos por eso estamos en un nuevo tiempo y por eso la situación actual es mucho mejor que la anterior por eso

y no debatir aquí esto no es apostar por el futuro señor iturrate eso es querer tapar el presente y el pasado

unas palabras que no son mías le voy a hacer

que no minimicen los actos de violencia callejera pues lo mismo me suscribo a lo dicho por el señor erkoreka

la conclusión y la vergüenza es que el partido nacionalista vasco el partido del gobierno no va a condenar los actos de kale borroka

de hoy el partido nacionalista vasco no va a condenar los actos de kale borroka el partido nacionalista vasco no va a mostrar su apoyo

y al gobierno que hagan todo lo posible para impedir nuevos actos de kale borroka y para impedir actos de enaltecimiento a eta esta es la conclusión y el drama actual que vive euskadi

el partido que sustenta al gobierno decide unirse a eh bildu para no condenar los actos de kale borroka en coherencia por otro lado con la actitud mantenida en el tiempo durante largos años y que impidió que pudiéramos acabar y derrotar a eta otra vez el partido nacionalista vasco de la mano de eh bildu impedir que este parlamento haga un ejercicio decente de democracia y condene los actos de kale borroka nosotros obviamente

de la transaccional hecho irrelevante denomina el portavoz de eh bildu a los actos de kale borroka hecho irrelevante es decir para los portavoces de la cosa extender el terror es un hecho irrelevante

debe ser también un hecho irrelevante sembrar el miedo que era el objetivo fundamental y sigue siendo el objetivo fundamental de la kale borroka es un hecho irrelevante marginar

la kale borroka es un hecho irrelevante expulsar a los nacionalistas y perseguir a la gente que piensa distinta y que no es nacionalista es para el portavoz

un hecho irrelevante hecho irrelevante denomina el portavoz de eh bildu a las acciones terroristas porque acciones terroristas es lo que son

en coherencia con su trayectoria de apoyo a eta en coherencia con su trayectoria de vocero de eta que es lo que ustedes son voceros

las acciones criminales de eta se niegan a condenar los actos de kale borroka y las denominan como hechos irrelevantes los representantes políticos de eta empujaron a jóvenes a practicar la kale borroka que tenía como objetivo

el terror esos jóvenes entraron en las cárceles como consecuencia actividad como consecuencia de que ustedes los han venido exculpando como consecuencia de que ustedes los han venido animando a que practicaran esas acciones jóvenes

por causas naturales en alguna cárcel esa es su responsabilidad ustedes actúan otra vez como voceros de eta y llaman hechos irrelevantes a hechos gravísimos que tienen como objetivo acabar con la democracia pero la pregunta en todo caso

al partido nacionalista vasco cuándo va a romper el partido nacionalista vasco con eh bildu cuándo va a romper
el partido nacionalista vasco con los testaferros de eta eskerrik asko maneiro jauna

legebiltzarkideok señora llanos mire la ponencia no es ningún parapeto para no decir porque lo que tenemos que decir lo que teníamos que decir lo hemos dicho en multitud de ocasiones en el parlamento y fuera de él y ya se lo he dicho

el día veintidós de marzo creo que fue en el pleno monográfico lo dijimos alto y claro como lo habíamos dicho en legislaturas anteriores y ahí está

aquel día también compartida con ustedes y con el partido socialista y sobre esa posición sobre esas bases sobre esos pilares se va a edificar

y no vamos a estar repitiéndolo cada vez que a ustedes les venga bien o necesiten contentar

necesiten acallar las críticas que desde su

yo entiendo los problemas que tienen ustedes entiendo y

de sus dolores y de sus lamentos casi como si fuesen en carne propia en las últimas semanas en los últimos meses porque

por parte de algunos opinadores por parte de algunas víctimas por parte de algunas asociaciones lo hemos vivido nosotros durante muchos años por parte de ustedes también de esos mismos y de ustedes también por lo tanto les comprendo perfectamente nosotros no tenemos ningún problema

para manifestar nuestra oposición a la kale borroka es que lo hemos siempre es que es tan absurda la crítica

por mucho que la repita usted con teatralización o sin ella no se la cree nadie nuestra postura con la kale borroka está clara pero nosotros decidiremos como actuamos en cada momento lo mismo que hacen ustedes si ustedes tienen apreturas

pero en una estrategia compartida compartida que se hace en espacios en los que se puede compartir no en los que se puede elevar el tono para cada unoreforzar sus posiciones iniciales y no avanzar hacia ninguna parte

es que es tan tan absurdo lo del rollo perdone ya el discurso de la ambigüedad y la equidistancia cuando ustedes están siendo acusados de lo mismo

la de ustedes la de ustedes según esos opinadores nosotros podemos votar y lo hacemos lo que no vamos a votar ni vamos a apoyar es su critica

impávido o impasible ante los actos de kale borroka que permite los homenajes a etarras que por cierto la propia audiencia nacional ha negado que haya habido homenajes a etarras

por parte de sus desgajados y el resto de satélites en esa estrategia no vamos a entrar

queremos hablar de eso aquí también pero después de haber hablado en ponencia y lo hacemos hablamos lo que no vamos hacer es participar en su estrategia

y mucho menos el partido mayoritario va a participar en una estrategia vergonzosa mentirosa calumniadora

con menos representación en este país que miente que calumnia y que intenta manejar la porquería con altavoz

ahora que antes como ustedes nosotros hemos recibido las mismas criticas que ustedes reciben ahora durante muchos años por parte de ustedes y hoy usted se ha querido sumar a ese carro precisamente

que tapar esas vergüenzas yo también le voy a terminar con unas palabras que no son mías es profundamente injusto que se proyecte una sombra de sospechas sobre el compromiso de quienes hacemos política en euskadi decía recientemente el señor sémper

decir que el pp poco más o menos que consiente no sé qué cosas que están sucediendo en euskadi

que somos prácticamente quienes apretamos el gatillo euskadi hoy es un lugar infinitamente mejor de lo que erá hace dos años y pico y estoy seguro que dentro de dos años va a ser infinitamente mejor de lo que es hoy

les entiendo perfectamente porque quitando pp de la frase y poniendo pnv es lo que han repetido ustedes durante años por eso les comprendo y comparto esta acusación esta denuncia que hacía el señor sémper por lo tanto yo termino

manifestaba ayer en madrid sobre este tema en lugar

o sobre las instituciones memoriales o sobre la kale borroka en este caso es más razonable y eficaz sentarse a
y establecer en más amplio acuerdo posible entre los dos gobiernos o entre las fuerzas parlamentarias para eso queremos reactivar la ponencia nada más gracias eskerrik asko

obliga usted a que intervengamos para puntualizar muchas cosas yo le decía en mi primera intervención o les me dirigía a ustedes diciéndoles que tienen una asignatura pendiente destruir

y usted hoy aquí ha demostrado bastantes cosas primero que tienen muchas asignaturas pendientes por resolver para democratizarse segundo

son absolutamente retóricas que no condenan el fondo la raíz el hecho violento que supone la kale borroka usted

casos sin ninguna importancia que eran cuestiones mínimas pues no

hay que denunciarla y si no nos ponemos si no partimos de esa raíz no podremos avanzar para

las causas que ya ha tenido vamos a ver creo que está absolutamente demostrado se demostró claramente que la kale borroka no era más que un complemento de la actividad de eta era una estrategia conjunta que lo que intentaba que iba destinada a sembrar el terror en las calles de euskadi

eta kale borroka cada uno hacía su papel unos tensionaban las calles

de terror que durante muchos años sufrimos en euskadi

que reiteradamente nos viene últimamente hablando de la ponencia de paz y convivencia como la panacea que va a resolver todas las cuestiones al respecto

lo que nos viene a demostrar es nos viene a reiterar en la posición que nosotros mantenemos sobre la ponencia de

nos viene a reiterar en la posición de que no consideramos que hoy por hoy es un instrumento que puede funcionar porque sobre la ponencia de paz y convivencia no hay no hay una base ética una base ética que nos puede incluir a todos una base ética de que partamos del rechazo y de la denuncia y de la condena de todas las clases de violencia

hoy nos ha demostrado que para él algunas violencias no son tan importantes ha empezado con la kale borroka veremos si es capaz de denunciar el señor arzuaga la violencia de los

si no condena la kale borroka no condena a eta dónde está el suelo ético que nos pueda permitir a todos dónde está el suelo ético que nos pueda permitir sentarnos en una de paz y convivencia insisto se ha demostrado hoy que no existen los mimbres que no existen las condiciones para que podamos partir y trabajar en pos de la paz y la convivencia si no hay una previa denuncia de la violencia

daukalako señora llanos nos dice que todos sabemos lo que es la violencia callejera bien claro que lo sabemos

por quemar contenedores la condena a un pirómano qué sucede que si hay una reivindicación política

años de cárcel es precisamente eso

refiriendo recientemente señora llanos su jefa de filas decía que ya nada es igual y por tanto las soluciones que exigen son muy diferentes

presuntamente aperturista de la señora quiroga supuestamente con un mayor apego o que reivindica al menos un mayor apego a la realidad dense un baño de realidad de realidad actualizada no es actual evocar estados de alarma ficticios

o que se hacen de forma residual o insignificante trece casos en el año dos mil

a cualquier tipo de paternidad del grupo que represento señor unzalu ha utilizado usted también el término residual para referirse a estos casos en cualquier caso

absoluto ejercicio de cinismo por su parte que me quiera pasar la prueba del algodón sobre violencias pretéritas

porque el problema que nos trae creo que no es el de la kale borroka es un problema impostado para tapar un problema real de índole interna

proyectado más hacia sus intereses particulares que a una cuestión de importancia o de interés que pueda tener o la ciudadanía o este parlamento

lógicas del pasado que ustedes se empeñan en mantener y eternizar zuen barruko tirabira horiek

arkaitz bellón izena duena puerto

jaun andreak señoras señores del pp quieren ustedes

ciertamente ustedes se están mostrando como los campeones de la perpetuación del sufrimiento en este país campeones de la vulneración de derechos humanos

campeones del odio de la intransigencia son ustedes los campeones

señoras señores del partido popular suya es la decisión de mantener esta política penitenciaria criminal suya es la responsabilidad directa de la muerte en prisión de arkaitz bellón blanco

tengo que empezar diciendo que usted señora presidenta ha permitido que un vocero de eta insulte a un partido político democrático hace
escasos minutos y tal cosa maneiro jauna me parece una absoluta vergüenza

hirugarrenean badakizu zer daukazun escribo estas líneas como viuda de juan carlos

tanto las víctimas de eta cuya actividad es la característica diferencial de euskadi como las víctimas de los gal y de otras agrupaciones terroristas

equiparar ambas realidades es inmoral difumina el terrorismo en un mar de supuestos agentes violentos desliza que las fuerzas de seguridad

a las nuevas generaciones la finalidad del terrorismo es el uso sistemático del terror es subvertir el orden constitucional

esto no tiene nada que ver con los abusos policiales el objetivo

el de la deslegitimación del terrorismo para sensibilizar

para trasladarles que no se pueden imponer ideas con violencia ahora se les invita a elegir a qué víctimas quieren escuchar es una maniobra perversa qué colegio de un pueblo controlado por la izquierda radical se va a atrever a llevar a una víctima de eta si en un principio el testimonio de las víctimas fue incluido en las

la inclusión del testimonio de víctimas de abusos policiales en ese mismo programa educativo terminará por generar resentimiento hacía una institución

de bien las fuerzas de seguridad fragmento de un artículo escrito ayer por laura martín viuda de garcía goena víctima de los gal

en este artículo compartimos los principios democráticos que defiende y estas son las razones evidentemente por las cuales presentamos la interpelación

moción que hoy defendemos finalmente hemos firmado una enmienda transaccional con el partido popular de tres puntos el parlamento vasco manifiesta que la educación es un pilar fundamental

y debe asentarse sobre principios y valores democráticos en el país vasco necesitamos además una escuela que trabaje en la deslegitimación del terrorismo a fin de preservar la memoria y la dignidad de las víctimas como premisa básica para construir una sociedad

el parlamento vasco apoya la continuidad del programa víctimas educadoras que impulsó

del terrorismo en las aulas vascas el parlamento vasco rechaza la introducción de las víctimas policiales

dado que esta propuesta del gobierno vasco desvía la atención y distorsiona la función primordial del programa original y diluye el terrorismo de eta la única violencia y justificada a día de hoy por determinadas organizaciones representantes políticos y partidos políticos esta es la transaccional que hemos firmado con el partido popular a quien agradezco su disposición el partido nacionalista vasco por su parte insiste nuevamente en mandarnos nuevamente al cuarto oscuro de la ponencia de paz y convivencia

por mucho que insista no lo va a lograr al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco les importan un bledo las víctimas policiales

el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco

utilizarlas el partido nacionalista y el gobierno vasco solo pretenden utilizarlas para diluir

del conflicto político el partido nacionalista y el gobierno vasco pretenden diluir los testimonios de las víctimas del terrorismo en la línea de lo que pretende

y convivencia el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco buscan quitar valor al discurso

el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco pretenden blanquear

el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco pretenden blanquear el daño provocado

por decirlo como lo dijo hace algunas semanas maite pagazaurtundua todas las víctimas para que no haya ninguna

podemos recordar que el partido nacionalista vasco se ha opuesto históricamente a todas las medidas impulsadas por los distintos gobiernos de españa que tenían como objetivo

se opuso a la aplicación de la ley de partidos se opuso a todas las actuaciones políticas y a todas las actuaciones judiciales

lo cual postergó la derrota de la banda y se opuso también a la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas por considerar que esa presencia era una medida abrupta puso todas las zancadillas que pudo

hace escasos minutos se ha negado a condenar los actos de kale borroka

impidió en una comisión que este parlamento instara a e i te be a programar diferentes programas en relación a las víctimas del terrorismo para darles voz

este es el compromiso del partido nacionalista vasco con las víctimas del terrorismo siguiendo esta línea coherente del partido nacionalista vasco

y para alcanzar los objetivos arriba señalados ahora plantea la presencia de las víctimas policiales que como digo solo busca diluir el terrorismo de eta importancia mezclarlo todo la presencia de las víctimas del terrorismo sí es indispensable puesto que sigue habiendo una parte de la sociedad vasca y representantes políticas e institucionales que siguen a día de hoy

criminal de la banda por eso es fundamental la presencia de las víctimas del terrorismo se trata de dar voz a las víctimas y deslegitimar la historia y las ideas de la banda terrorista nos dirán algunos que todas las víctimas merecen reconocimiento y que todas tienen derecho a la justicia y nos dirán que ninguna violencia ha tenido

no es este el asunto el asunto es la equiparación que el gobierno vasco pretende

no hay ningún representante político no hay ningún partido político que defienda tal cosa mientras sí hay quien defiende el terrorismo de eta por eso es

del terrorismo en las aulas vascas por esto defendemos que no se introduzca el testimonio de las víctimas policiales porque su objetivo real es el que he señalado diluir el terrorismo de eta y sustentar la teoría del conflicto

este es el objetivo por lo tanto de la moción planteada y de la transaccional que hemos firmado hay que destacar evidentemente el importantísimo papel que tiene la comunidad educativa un papel que desgraciadamente no ha llevado a cabo

en los últimos tiempos pero el papel de la comunidad educativa es absolutamente fundamental para lograr la deslegitimación terrorismo el papel de la educación el importantísimo papel de la educación el importantísimo papel que podrían ejercer los profesores y que deben ejercer los profesores y que estoy seguro que terminarán ejerciendo los profesores y que deben en todo caso ejercer

que podría ejercer también una asignatura como educación para la ciudadanía para defender los valores democráticos

y nuestros marcos de convivencia para explicar a los jóvenes que las leyes pueden cambiarse obviamente pero que tienen que seguirse los procedimientos establecidos para hacer ver a los jóvenes vascos que deben utilizar siempre la voz y la palabra

para hacer trasladar a los jóvenes vascos que hay que comprender al diferente el pluralismo los derechos humanos el valor de la diferencia la tolerancia ese es el importantísimo papel que tiene la educación que tiene la comunidad educativa y que tienen los profesores

la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas por lo tanto esta es la transaccional que nosotros hemos firmado y que defendemos porque estamos convencidos
en este asunto tenemos razones y tenemos razón para poder defenderlo gracias eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta señorías

como ha anunciado el proponente ha firmado una enmienda de transacción porque efectivamente defiende una escuela vasca que eduquen valores creemos

fundamental de nuestra sociedad y debe asentarse sobre principios y valores democráticos necesitamos una escuela proactiva en la defensa de esos valores que defendemos

de nuestra historia una educación al servicio de la convivencia y de la deslegitimación del terrorismo

en su día apoyamos el programa de testimonios de víctimas en la escuela un programa con un recorrido escaso tenemos que ser serios un programa del que tuvimos muchos titulares de prensa provocó mucha polémica pero realmente su recorrido en la escuela

fue muy limitado esa es la realidad pero en todo caso nosotros apostamos por la voluntad de un gobierno que quería llevar el testimonio de las víctimas

a las escuelas vascas nosotros seguimos pensando que es necesario apostar por esa deslegitimación del terrorismo en la escuela creemos como dicen los planes del gobierno que hay que combatir en nuestra sociedad los dogmatismos

la escuela tiene que combatir en primera línea el fanatismo el dogmatismo los posicionamientos sectarios la necesidad de respetar

de los demás opinar en cualquier rincón de nuestro país

pero no basta con desarrollar propuestas de resolución de conflictos analizar todas las violencias y la conculcación de los derechos humanos como si nos encontrásemos en cualquier otro lugar del mundo por supuesto que es necesario

no sea capaz de educar en relación con el posicionamiento

cualquiera de las violencias claro que necesitamos una escuela que eduquen valores

que no manipule queremos una escuela que eduque en la memoria que construya un relato veraz

nosotros cuando afrontamos estos programas lo hacemos igual que lo puede hacer otra comunidad otro país en otro hemisferio eso en cuanto a las reglas generales pero nosotros tenemos que afrontar un problema específico

lo que nosotros echamos de menos en los planes del gobierno no abordar esta cuestión como un problema específico que ha sacudido nuestra sociedad

y que efectivamente es la que fundamentalmente condiciona la construcción de una convivencia

al futuro queremos una educación que no aliente esa teoría del conflicto y por eso nosotros aquí reclamamos

una educación que aliente la teoría del conflicto en la que encuentran acomodo quienes justificaron en su día la violencia quienes siguen justificando su pasado de complicidad con el terrorismo repartiendo culpas tratando de diluir su propia responsabilidad es alentar en vano

en valores creemos que es un error que va en la dirección contraria alentar la teoría del conflicto da alas oxígeno a aquellos que quieren permanentemente justificar el terrorismo común a la violencia de respuesta aquellos que quieran presentar el terrorismo en euskadi como una violencia de respuesta a otras violencias

eso es lo grave ese es el riesgo más importante que corremos hoy con estos planteamientos del gobierno con losque

hablando de todas las víctimas de todas las violencias y llevando testimonios sin saber exactamente para qué sin saber cuál es el objetivo sin conocer exactamente qué es lo que se persigue e

estamos solo solo enredándonos en la estrategia de quienes quieren repartir culpas para diluir su propia responsabilidad creo que el modulo que presenta el gobierno llamado adi

y convertir los programas de testimonios de víctimas educadoras en otra cosa en otra cosa distinta hablan de actualizar los programas pero hablan de testimonios de violaciones de derechos humanos en general no reconocen nuestro problema especifico no reconoce el verdadero reto que tiene esta sociedad no reconoce el verdadero reto que tiene esta sociedad para construir la convivencia

nos parece que el gobierno quiere no un plan de verdad que afronte los retos que necesitamos desde la escuela para combatir la justificación del terrorismo para deslegitimar el terrorismo sino que lo que plantea es un plan tranquilaconciencias yo creo que

la conciencia del gobierno el papel lo aguanta todo

pues finalmente este plan cabe en cualquier cajón porque el recorrido que tendrá será corto será corto porque es un plan de miras cortas porque nosotros nos preguntamos no habíamos coincidido todos en que era necesario

porque teníamos que combatir todavía

desde determinados sectores siguen empeñados en justificar la violencia para la consecución de objetivos políticos no necesitábamos dar una respuesta aquella voz de alarma que surgió del ararteko cuando dijo que el dieciocho por ciento de los jóvenes vascos

justificaba el terrorismo de eta justificaba los asesinatos para la consecución de fines políticos no necesitábamos dar una respuesta y se entendió que el testimonio de las víctimas formaba parte de todo un paquete de medidas que necesitábamos para deslegitimar

como una acción especifica no diluida entre muchas otras especifica porque teníamos un problema esta sociedad no tiene un problema no hay aquí señores en esta cámara

no conocemos esos datos que afectan a una parte de nuestra sociedad especialmente a los jóvenes coincidíamos en que la escuela tenía que hacer un trabajo

el testimonio de víctimas de abusos policiales de excesos policiales o de vulneraciones de derechos humanos producidas

antes de nuestra constitución qué se pretende yo quiero que el pnv nos salga aquí y nos diga qué se pretende hay alguien qué justifique

combatir la legitimación de esa violencia hay alguien hay algún sector de la juventud vasca que legitime la violencia policial el exceso la vulneración de derechos humanos hay quien lo justifica entre la juventud

no es verdad luego nos tendrán que explicar para qué por qué si no hay nada que contrarrestar en ese ámbito

no hay nadie que esté dispuesto a justificar esa vulneración de derechos humanos

cuando se refiere a situaciones anteriores a la aprobación de nuestra constitución anteriores a la democracia no tienen ningún sentido excepto que se pretenda

de la reconciliación por la existencia de un conflicto que nos enfrentó solo tiene sentido si el pnv está dispuesto a dar cobertura y a dar aliento a la teoría de quienes quieren presentar el terrorismo de eta como un terrorismo de respuesta de respuesta a una supuesta violencia del estado de supuesta a otras violencias de represión que eso lo único que va a provocar no solo es confusión

lo que va es justo en la dirección contraria por eso creo que no estamos ante un tema menor no estamos ante un tema menor creo que el pnv aquí tiene que dar una respuesta la consejera debería salir aquí

hacer qué objetivo persigue porque no tiene ningún sentido no hay nada que apoye en este momento tergiversar confundir para alentar

sailburu andrea legebiltzarkideok los socialistas defendemos una educación integral en valores democráticos

y más concretamente su departamento de educación liderado por la consejera celaá alcanzara un acuerdo muy amplio con los agentes educativos alcanzara

referente imprescindible a la hora de hablar de las cuestiones que hoy estamos tratando aquí y ese plan

tenía objetivos muy concretos dar a conocer entre los escolares nuestro pasado de violencia y terrorismo educar en la memoria

educar para la convivencia democrática y combatir la justificación de la violencia y vulneración de los derechos humanos

de las víctimas educadoras que por primera vez en nuestra historia

el terrorismo totalitario que hemos padecido durante tantos años un programa

porque lo consideraban como antes los gobiernos de ibarretxe demasiado arriesgado

posteriormente en junio de dos mil doce ejecutando una resolución de esta misma cámara aprobada por setenta y cuatro

aprobó un decreto de reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos

política que se circunscribía a los hechos ocurridos entre los años

a partir de la publicación de ese decreto las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales

para incorporarse al programa de víctimas educadoras personas que fueron víctimas de hechos terribles sin justificación alguna desde una perspectiva democrática personas a las que se debía

un reconocimiento público que ha tardado muchos años en llegar y un reconocimiento público a todos los efectos y en todos los ámbitos también en el educativo y esto no es como dice upyd y también dicho el portavoz del grupo popular diluir la gravedad del terrorismo de eta

esto es aprovechar las oportunidades que nos ofrece el fin del terrorismo

a partir de una memoria inclusiva esto es en definitiva recorrer el camino que nos lleva a una democracia más plena con sus leyes sus instituciones y sus reglas de juego

porque no puede equipararse vulneraciones de derechos humanos que son de naturaleza distinta ni utilizar a las víctimas de violencias policiales o parapoliciales

a avalar la teoría de un conflicto entre dos bandos para justificar el terrorismo que nos ha tocado vivir durante tantos años es por eso

quienes hoy abogan por esperar a que construyamos un relato común sobre la vivencia señor ubera

cuando ustedes denuncien a eta y a quienes apoyaron el terrorismo de eta esto solo se conseguirá cuando ustedes reconozcan que aquello no ha servido nada más

dolor sufrimiento y división en la sociedad vasca la mayoría de nuestra sociedad está construyendo su relato identifica perfectamente entre víctimas y victimarios y no van a engañar a nadie si la memoria de todos lo que pretende es equipararnos la gravedad específica del terrorismo queda perfectamente definida en la ley de víctimas que este parlamento aprobó

sino consecuencia de un proyecto totalitario y excluyente que trataban de imponer utilizando la sangre de personas inocentes las víctimas para aterrorizar al conjunto de la ciudadanía buscando su desistimiento esto es lo que hay que explicar a los escolares

que en euskadi ha funcionado durante muchos años un terrorismo totalitario que ha tratado de blindar las libertades

a una convivencia integradora pero esto no es obstáculo para explicar también que en euskadi como en el resto de españa

que cometió determinadas atrocidades que no hay porque olvidar ni los delitos que se cometieron para tratar de eliminar

también esa memoria debe estar en la mente de nuestros escolares que tienen derecho a conocer nuestra historia

tienen derecho a conocer toda nuestra historia que ha abundado en vulneraciones graves de derechos humanos para ser conscientes de lo que no puede volver a repetirse

reconociendo a las víctimas de violencia policía repito en cumplimiento

de este parlamento no queremos por tanto enfrentar a quienes han sufrido vulneraciones distintas de derechos humanos queremos sumarlos queremos que personas formadas y preparadas para ello personas que han sufrido el zarpazo de la violencia transmitan a nuestros niños y niñas la necesidad de reconocimiento y justicia para ellas como garantía

no volverá a repetirse en nuestra sociedad este es el sentido de la enmienda que hemos presentado y que consta en dos puntos en el primero se subraya la pena vigencia de una educación para convivencia en los centros educativos de euskadi

de violencia y terrorismo la memoria como base para construir un futuro con libertad y justicia

de cualquier tipo de quebrantamiento de derechos humanos apoyamos con todas las cautelas sobre el plan presentado por el actual gobierno la continuidad del programa de víctimas educadoras desde una perspectiva de pedagogía democrática integral seria rigurosa y equilibrada

que el partido nacionalista vasco practicó el silencio en las aulas

que los gobiernos del partido nacionalista vasco practicaron silencio en las aulas eso no es cierto y lo saben porque tuvo un programa piloto del cual ustedes tuvieron informe bakerako urratsak

ya sé que esto es volver al rifirrafe y no quería hacerlo incluso mucho menos con ustedes porque creo que

que precede o que es consecuencia

tanto de bakerako urratsak como de las víctimas educadoras queda un paso más incluyendo a otras víctimas con las que ustedes están de acuerdo creo que no es motivo

entre nuestros partidos políticos pero eso sí me gustaría aclararlo porque parece ser que es el partido nacionalista vasco el que siempre se ha negado a que las víctimas y sus testimonios vayan a las aulas

respeto para la comunidad escolar para el gobierno para que desde el acuerdo sigan trabajando en la promoción de la cultura de la paz de la convivencia y el encuentro

respeto para el trabajo desarrollado por tantos profesionales y centros escolares durante muchos años

agradezco nuevamente al grupo popular la firma de esta transaccional y la inclusión expresa de nuestra negativa a que

hemos explicado bastante a fondo las razones por las cuales consideramos que no deben incluirse el testimonio de las víctimas policiales en las aulas y al partido nacionalista vasco se le ha pedido expresamente que explique cuáles son las razones pedagógicas para llevar a cabo esta iniciativa y lo máximo que ha dicho la representante del partido nacionalista vasco es que en fin no quiere entrar en polémicas como si esto no fuera

aquí estamos para parlamentar y para comparar los argumentos de unos con los argumentos de otros y para intentar convencernos incluso unos a otros incluso para dejarnos convencer también llegado el caso pero para que uno pueda ser convencido lógicamente

del resto de grupos pero si hay uno de los grupos que dice que no quiere polemizar pues es complicado es muy complicado nosotros en todo caso tampoco hemos traído esta iniciativa para que haya polémica sí queremos que haya debate y puede haber polémica

nos parece que es un debate ciertamente interesante y porque queríamos expresar en este parlamento cuál es la posición en relación a este asunto todo esto lo décimos con todo el respeto ustedes no explican las razones

en absoluto todas las víctimas tienen los derechos hay que respetarlas hay que comprender la comunidad educativa etcétera etcétera pero no explican las razones por las cuales introducen o pretenden introducir a las víctimas policiales y nosotros sí que vemos claro cuál es su propósito

conllevaría y pensamos que la presencia de las víctimas policiales conllevaría a la defensa o al impulso de la teoría del conflicto político

es una especie de enfrentamiento da la sensación de que aquí hubo una especie de

y pretenden también diluir el terrorismo de eta y pretenden también quitar valor a las víctimas del terrorismo yo creo que esto es lo que realmente se pretende quitar valor al discurso de los agredidos

y evidentemente hace falta una escuela proactiva

silente que es la que en muchas ocasiones hemos tenido una educación al servicio de la convivencia que deslegitime el terrorismo de eta y no podemos olvidar que es aquí donde existen representantes políticos que defienden la trayectoria de eta es en euskadi esa es la característica diferencial de euskadi que aquí hay representantes políticos que defienden esa trayectoria y por eso es importante la presencia de las víctimas del terrorismo

además de educar en valores además de explicar que hay que defender los derechos humanos además de defender que hay que respetar la convivencia además de todo eso por eso es importante la presencia de las víctimas del terrorismo por lo tanto no se trata de repartir como ustedes pretenden de sustentar la teoría del conflicto político o de diluir el terrorismo de eta que es lo que creo que ustedes defienden y pretenden iniciativa por lo tanto la presencia de las víctimas del terrorismo sí es indispensable porque aquí sí ha habido un caldo de cultivo para sustentar

de las víctimas del terrorismo en fin evidentemente la educación es fundamental y no solo la educación como decía la portavoz del grupo eh bildu hay que trabajar en las familias hay que trabajar en la sociedad hay que trabajar

en los diferentes ámbitos pero sí que llama la atención que la representante de eh bildu

o incluso que hable de empatía de autocrítica o de respetar al que piensa distinto si ustedes ni siquiera han condenado el terrorismo de eta

al resto si ustedes no condenan a eta si para ustedes que los delincuentes estén en las cárceles es un acto de violencia cómo vamos a entendernos por lo tanto si quieren realizar ustedes una aportación

lo primero que tienen que hacer es condenar a eta y condenar su trayectoria y todavía no lo han hecho

debates que ya hemos tenido hemos defendido por lo tanto esta transaccional me parece absolutamente fundamental hay un gran número

insisto es trabajar la educación en valores que no se mantengan en silencio los profesores que hablen alto y claro y que además de todo esto

las víctimas del terrorismo para dar su testimonio y puedan contar también la verdad de lo ocurrido por eso mantenemos nuestra enmienda transaccional gracias eskerrik asko

señora vaquero este plan bases y proyectos del plan de paz y convivencia en el ámbito educativo

si ustedes aprueban un plan y nos dicen

ustedes ya han anunciado que este programa lo van a llevar a adelante no está o lo tienen todavía en discusiones la ponencia con bildu este es un plan que van a llevar adelante y además han anunciado que sustituyen el plan de

educadoras que planteó el gobierno anterior lo sustituyen por otro distinto

víctimas de todas las violencias y se va a hablar sobre la violencia y la vulneración de derechos humanos en general y para eso van a introducir testimonios de víctimas de abusos policiales

pues esto ya es una decisión del gobierno ya lo han anunciado tampoco podemos

las acciones y las determinaciones y las decisiones del gobierno aquí en esta cámara o sea cuando discrepamos de ustedes nos tenemos que ir al cuarto oscuro este que llaman ahora

en el que de vez en cuando salen papeles de lo que hablan pero lo deben hablar fuera de la ponencia al parecer ustedes fuera de la ponencia hablan con bildu

largan ustedes muchísimo fuera de la ponencia en los medios de comunicación los demás parece ser

en esta cámara entonces para qué está esta cámara no se trata señora vaquero de buscarle empatía con el dolor es que esto no necesita tantos planes involucrar a toda la comunidad educativa buscar la empatía con el dolor de las víctimas es fácil

el problema que tenemos aquí no es solo la necesidad de buscar la empatía con el dolor de la víctima

al fondo del problema asumir que tenemos un objetivo que esta sociedad

desterrar el miedo el terror pero combatir el dogmatismo y el fanatismo y deslegitimar el terrorismo ese es un problema específico

específico y solucionar ese problema específico necesita decisiones claras tener claro el objetivo y aquí no son ustedes capaces de bajar aquí y explicarnos cuál es el objetivo

trayendo otras víctimas víctimas de los abusos policiales no nos lo han explicado porque estaba claro cuál era el objetivo de las víctimas del terrorismo necesitábamos combatir

de los escolares vascos estén dispuestos a justificar el terrorismo de eta me quiere usted bajar aquí a decir qué tiene que combatir el testimonio de las víctimas policiales qué caldo de cultivo hay que respalda

los excesos policiales la violencia por parte de la policía en aquellos

usted me puede decir aquí si esto no está alentando a quienes quieren construir esa teoría

del conflicto y dibujar el terrorismo como una violencia de respuesta

en el dos mil catorce hablan de la legislación española como una legislación criminal pero qué lenguaje democrático podemos hablar en ese cuarto

qué lenguaje si nos dicen que la política penitenciaria española que es la más garantista de europa es una política criminal pero ustedes conocen

la nuestra que es la más avanzada la consideran una política criminal la de nuestro país

además de buscar la empatía con las víctimas y el dolor no se trata de ir a la raíz del problema no se trata de deslegitimar y desarmar los argumentos de quienes tratan de justificar

no se trata de eso no se trata de prestigiar la democracia y sus valores no se trata de asentar la convivencia sobre principios éticos no necesitamos que esta sociedad mire al futuro

construyendo un relato veraz de lo que nos ha pasado no se trata de eso

de seguir en el alambre tratando de dar gusto a quienes permanentemente quieren de manera maniquea falsear nuestra historia

la presencia de las víctimas en las aulas esto implica lógicamente que antes ni estaba regulado ni estaba impulsada

si quiere como usted ha dicho olvidemos la confrontación y vayamos a lo concreto vayamos a lo que hoy tenemos sobre la mesa para votar vayamos a lo concreto vayamos

encima de la mesa una transacción de upyd con el pp una transacción del pnv con eh bildu

de estas tres la única propuesta que defiende la continuidad delprograma de víctimas educadoras con la inclusión de las víctimas incluidas en el decreto de junio de dos mil doce es la nuestra la enmienda de totalidad del partido socialista en la moción de upyd a pesar de las cautelas que son muchas que nosotros tenemos el programa que ha presentado el gobierno somos los únicos que nos definimos a favor de que ese programa siga funcionando somos los socialistas los únicos que hoy

nos vamos a definir de esa manera el pnv sin embargo ustedes lo que han hecho es diluir el apoyo al programa en una declaración de principios que es

para nada la cuestión y luego remitirnos como ya ha está siendo reiterativo semanas a una ponencia de paz y convivencia que en la que es posible que se queden solos

o sea que igual se quedan ustedes solos en esa ponencia porque la verdad que con su actitud no están haciendo para que nosotros nos vayamos acercando hacia ello señora uriarte su gobierno el gobierno del que usted forma parte

cuando el grupo que tiene que sustentarle a usted le tiene que apoyarle elude el apoyo explicito una transacción precisamente con quienes claramente se oponen a la continuidad de un programa que usted misma ha impulsado que usted misma ha presentado

tienen ustedes un grave problema cuando ese grupo prefiere ir con quienes no apoyan el programa antes de hacer un apoyo explicito como por ejemplo

lo hacemos en nuestra enmienda transaccional porque hoy estamos escribiendo un párrafo más de la página que ustedes señores del gobierno señoras del gobierno están escribiendo una página donde queda claro

y de iniciativa y que en repetidas ocasiones esa falta de liderazgo y de iniciativa tiene que ser asumida por la oposición y más concretamente por los socialistas

de que su grupo el grupo que les sustenta les apoyen explícitamente y pasando el esto a mí me parece que el

me gustaría decirle que las víctimas

no son unas víctimas con una ideología concreta no responden a una ideología concreta responden son víctimas porque

parapolicial y ustedes creo que también sobre esas víctimas tendrían que tener esas víctimas tendrían que tener su apoyo para que también sean escuchadas allí donde se educa a las personas donde se educan

a las futuras generaciones por eso yo creo que ustedes tendrían

no ver las cosas de una manera lineal sino en el contexto que estamos hablando estamos hablando en un contexto de un decreto

que fue aprobado en junio de dos mil doce y que deja las cosas bien claras

no obstante nosotros vamos a votar a favor de los dos primeros puntos

a los dos primeros votaremos a favor y votaremos en contra del tercero de la enmienda transaccional de eh bildu y el pnv y por supuesto votaremos a favor
de nuestra enmienda de totalidad muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

inora eramaten entiendo que el miedo del partido popular

y puede dirigirse a ocultar determinadas vulneraciones de derechos humanos porque se intente justificar la de otras pero eso es no tener una visión universal de la vulneración de derechos humanos además ustedes hacen una distinción de víctimas dependiendo del victimario y eso poco respeto ofrece a las víctimas porque la violencia ejercida hacia unas víctimas sí puede ser

y ya lo sentimos pero lo hemos repetido mil y una veces que

pero aparece en la página veintiuno de adi adian y la puede leer usted mismo

y lo defendemos y está incluido en el plan la dignidad humana la dignidad humana es

está por encima de cualquier razón política y cualquier razón de estado y eso está incluido dentro del plan y lo que no vamos a hacer es dar legitimidad a unas víctimas frente a otras dependiendo de cuál sea el victimario eso es lo que no vamos a hacer

y ustedes dicen que al cuarto oscuro y a esa ponencia que está en secreto vayan acudan

trabajen en la ponencia tratemos estos temas en la ponencia con qué no están de acuerdo

la comunidad educativa y el gobierno díganlo en ponencia lo que no sirve de nada es hacer esta escenificación que para lo único que sirve es para titulares de prensa y claro upyd está cómodo porque al fin y al cabo ya sabe

unos cuantos votos pero verdaderamente señor maneiro merece la pena entrar a estos debates estériles por una docena de votos